ambos profesores es una definición adecuada porque lo que se está planteando con el punto que

es la generación de un nuevo espacio de derecho global es modificar las leyes para ajustarlas a las necesidades no a las necesidades de la sociedad en este caso de los pueblos de europa de los ciudadanos y ciudadanas de europa sino

de las multinacionales que necesitan generar un espacio más cómodo de comercio para seguir acumulando más beneficios

este espacio nuevo de derechos global que pretende imponerse sobre la soberanía de los estados sobre la soberanía de la propia

es un espacio caracterizado por la impunidad y por la asimetría

y asociado esto de la impunidad a la asimetría al concepto de derecho global no cabe sino preguntarse en qué queda el derecho

que se manifiesta asimétrico es decir desigual y que se manifiesta impune ante lo que cometan o ante lo que realicen determinados

no parece que se ajuste al principio de derecho que toda sociedad democrática quiere para sí mismo

no es casualidad que hayamos esperado a que llegara este día para debatir este punto porque

la comparecencia con la consejera fue una comparecencia que se materializó hace ya más de un mes

que en estas elecciones en las que seguramente a los candidatos y candidatas de todas las formaciones políticas aquí presentes y otras no presentes en esta cámara les vamos a oír decir cosas

relativamente parecidas y desde luego ninguna malsonante nos parece que traer este debate aquí da un contenido que probablemente en la campaña puede pasar desapercibido es muy probable

cosas como que euskadi tiene que tener más peso en europa que nuestra voz se tiene que escuchar más que nuestras decisiones tienen que respetarse más

todo eso que seguramente incorporará el discurso diario el discurso corriente de cada formación política es algo que se pone seriamente en entredicho con esto que estamos hoy aquí eso es una opinión personal por si se quiere una opinión del grupo parlamentario que hoy represento aquí de eh bildu es difícil

de una europa con más derechos de un espacio generador de derechos para el conjunto de la ciudadanía europea de una profundización democrática de una voz propia en europa cuando se apoyan cuando se manifiestan posiciones favorables

los derechos de la ciudadanía para ponerle en bandeja un área de comercio más grande

de poca importancia yo creo que en eso también podríamos coincidir todos y todas de hecho en la comisión así lo manifestaron

más de un interviniente por los grupos parlamentarios parece que este acuerdo es muy importante para nosotros también

sin embargo esta decisión es tan importante como esa

todo antidemocrática en este caso se nos lleva a un marco de comercio antidemocrático a un marco de comercio que pretende regular cómo tenemos que vivir cómo tenemos que producir y sobre todo cómo

sinceramente para nosotros la firma de este acuerdo la hipotética firma de este acuerdo la previsible firma de este acuerdo es el retorno a esa europa de la que todos ustedes seguramente dicen no querer retornar la europa que era únicamente era un espacio de comercio la europa que primaba el flujo del movimiento del dinero a la generación de derechos para los ciudadanos es decir la fotografía de la comunidad económica europea y si alguno se pone nostálgico o vetusto incluso la de la ceca la de la comunidad económica del carbón y el acero eso es en lo que va a quedar europa

de estados unidos porque no tiene nadie por qué pensar que lo que han hecho

no tenemos porqué pensar que las consecuencias que han sufrido los pueblos

no se puede defender que el carácter geoestratégico es tan importante como para que generemos un área de relación preferente con estados unidos a la emergencia del gigante asiático de china cuando se oculta que lo que se va a hacer es generar un espacio en europa donde van a existir pequeñas chinas

tan mermadas en derechos como la que allí se puede denunciar en los derechos sociales y en los derechos laborales

del poder político también por parte de las transnacionales señalaban en la comparecencia un elemento que es altamente definitorio de nuestra oposición a este acuerdo pero también creemos de la percepción que se puede tener sobre el mismo es a la vez un mecanismo regulatorio

pero siempre la balanza se desequilibra al mismo lado es decir allá donde las transnacionales necesitan más regulación para sus intereses se regula más

allá donde las transnacionales necesitan menos regulación es decir en los estados en los niveles de protección de los estados para sus mercados interiores se desregula también otra vez en beneficio de las transnacionales y en perjuicio de los y las ciudadanas

y también se dijo en la comisión este es un debate entre dos modelos y es bastante evidente cuál es aparentemente la posición que se va a sostener en esta cámara porque supongo que no será muy diferente a la que se ha sostenido hace dos días en el congreso de los diputados y la que se ha podido sostener incluso en la comparecencia de la interpelación con la consejera que tuvo lugar hace un mes

la apuesta por mantenerse dentro de los límites de un marco económico que prima el interés de los

o quienes planteamos romper con esa dinámica para generar espacios propios de decisión de rescate de nuestra soberanía y sobre todo de empoderamiento ciudadano y social confrontando sí pero haciéndolo así porque de otra manera entendemos que poco futuro nos queda a todos y a todas pensemos como pensemos y nos situemos más o menos cómodo en uno u otro modelo pero

en la medida que no ha habido enmiendas y que las posiciones sostenidas en la comisión el otro día no parecían partidarias

no descarto la posibilidad de señalar algunas cuestiones que como digo por encima de la valoración que cada formación política tenga sobre este acuerdo transatlántico de comercio e inversión que podríamos compartir y creo sinceramente lo digo que la ciudadanía puede entender como razonables parece evidente que ha sido un proceso opaco un proceso

cerrado y oculto a la ciudadanía el propio presidente de la comisión europea reconocía tener pánico a la socialización de este acuerdo

para que los mercados no se agitaran pero sí sabemos porque por fortuna

sacar cierta información que ha habido más de ciento noventa y dos reuniones con los lobbies en favor de las transnacionales los lobbies de la empresa farmacéutica los lobbies

eso sí lo sabemos pero no porque nos hayan informado de manera directa no ya a nosotros a ningún gobierno ni siquiera parece

esa es la realidad y yo creo que ahí desde luego podíamos coincidir

no parece la mejor manera la de recurrir a elementos de opacidad pero hay otro elemento que también quiero señalar uno es

qué supone la equiparación normativa con los estados unidos estados unidos no ha firmado el protocolo de kioto creo que en esta cámara la gran mayoría está a favor

les permite a ellos trabajar aquí como si nosotros no lo hubiéramos firmado y por tanto contaminar aquí como si nosotros no lo hubiéramos firmado como si nuestro compromiso quedara en papel mojado ellos no han firmado estado unidos la convención de la unesco sobre la diversidad cultural y eso supone también de facto

espero que no lleguen al nivel de situarnos en reservas como a los habitantes primigenios de los estados unidos de américa no han firmado tampoco la convención de la unesco la diversidad cultural pero tampoco la de las naciones unidas sobre biodiversidad y no han firmado muchas de las recomendaciones y declaraciones de la organización internacional del trabajo ese es el marco al que nos vamos a igualar un marco que tiene efectos devastadores

se me decía en la interpelación con la consejera que se iban a crear muchos empleos

las previsiones que se han utilizado para vender como bueno este acuerdo han sido rebajadas en un noventa por ciento por la propia comisión europea

antisistemas por la propia comisión europea es decir donde ellos situaban en cuatro millónes la creación de empleo cuatro millónes de puestos de trabajo

pero es que además tenemos los ejemplos el acuerdo de estados unidos con corea

el acuerdo el llamado aléna con méxico y canadá supuso

cuando lo que preveían era crear veinte millónes de puestos de trabajo se hablaba de méxico como referente yo entiendo que alguien defienda a méxico como referente si se fija solo

de sus clases populares desde luego es un ejemplo al que seguramente nadie quiere acercarse no en vano y probablemente por eso y como consecuencia de ello hace veinte años surgió una experiencia muy digna que se llamó ejército zapatista de liberación nacional y lo hizo a raíz de la firma de este acuerdo porque también ahí

y tiene la ruina de sectores importantes de la ciudadanía en definitiva un empeoramiento sustancial y total de la calidad de vida y una pérdida de soberanía en esta cámara en la que

entorno a esta cuestión pero también creo que todos y todas somos conscientes de que hay una mayoría que dice sostener la necesidad de más soberanía todos debiéramos saber que

nos impiden tomar decisiones nos impiden ejercer el derecho a decidir y es responsabilidad de todos y todas que eso no se haga y que si se hace se haga con nuestra posición contraria porque si no no valdrá de nada reclamar espacios de soberanía para la vez cederla todo

y hay otros elementos en los que también podríamos estar de acuerdo no parece razonable crear un consejo de cooperación regulatoria donde se ejecute siempre el principio de norma más favorable para las trasnacionales

pero aún y en el supuesto de que esas leyes no les sean del todo favorables le dejamos la posibilidad de que se acoja al principio de norma más favorable de entre las existentes para que sus beneficios

y junto a esto y esto ya lo señalé también en la interpelación y por eso no me reiteraré demasiado en la eliminación de medidas de protección de los mercados interiores la eliminación del principio de precaución pondré solo un ejemplo o dos uno el del fracking

pero si permitimos como ha pasado en canadá que este acuerdo salga adelante nos impondrán la explotación de gas por esquisto

y esa es la realidad que tendrá que ver con lo que cada uno de nosotros y nosotras votemos y digamos pero hay otro ejemplo el que tiene que ver con la seguridad alimentaria todos exigimos calidad

sin embargo con este acuerdo todo eso quedará a un lado quedará eliminado porque podremos introducir todas las políticas de estados unidos desde las que permiten el hormonar ganado vacuno sin control hasta las que permiten eliminar etiquetaje de los organismos genéticamente modificados todo eso y hay otro elemento

allá donde las trasnacionales entiendan que su margen de beneficios se limita recurrirán a tribunales creadas por entidades privadas que superaran la legitimidad y la soberanía del propio estado

la apuesta por el desarrollo humano sostenible cuando vamos o cuando se va a apoyar un acuerdo trasatlántico de comercio e inversión que pasa por encima de cualquier desarrollo humano sostenible y que pasa por encima incluso de la lógica y necesaria priorización y jerarquización de los derechos humanos sobre los derechos comerciales

muchas gracias señora presidenta señor matute se ha superado hoy usted a sí mismo y la demagogia

la verdad es que cada intervención suya posterior va a ser complicado que pueda superarse a la que ha tenido hoy

sí es que alguna vez se llega a firmar ese tratado desde luego no se trata de

le voy a explicar porque por lo visto como usted no sabe eso

ha debido de leer alguna página web sobre este tema

pues le voy a decir de dónde viene el posible tratado si es que alguna vez existe ese tratado

cumbre de estados unidos europa del dos mil once se crea un grupo de trabajo de alto nivel

sobre empleo y crecimiento para que plantearan

para que se pudiera crear más empleo tanto en estados unidos como en europa en dos mil trece ese grupo hace un informe y dice que estaría bien

de comercio amplio y ambicioso y es lo que propone y desde entonces ha habido reuniones entre europa y estados unidos para ver si se llega a ese acuerdo yo no sé los datos que usted ha dado de dónde se los ha sacado de dónde se los ha inventado yo le voy a dar los datos pese

dice pues si usted entra en la página web de la comisión europea la verdad es que lo tiene ahí no sé de dónde se inventa esos datos

cuando se hablaba de crear empleo y los puestos de trabajo que se podían crear

entre treinta y seis mil y ciento cuarenta y tres mil puestos de trabajo no de los cuatrocientos mil que dice usted que la comisión ha dicho ni del millón de

esos son los datos que se barajaron y que el crecimiento del pib se podría incrementar en europa

millónes de dólares no en esas cifras que usted nos ha dado pero

algunos datos y también si usted puede me los explique verá tanto españa como el país vasco

aparte de la unión europa el principal país al que exportan es a estados unidos no sé si usted es conciente

que nuestras empresas exporten a estados unidos en concreto le puedo dar algunos datos

en dos mil trece más de cuatro mil quinientos empresas españolas no sé si según usted son

supongo que el grupo mondragón es otra transnacional para usted todo son transnacionales

y el país vasco en el año dos mil trece a estados unidos exportó

de euros no sé si también hay que cerrarlos o ya cerramos todas las empresas y no vendemos nada a nadie

las empresas vascas son las que crean empleo aquí son las que dan empleo aquí luego nos lo explica hay que cerrar el grupo mondragón no hay que comprar nada al grupo mondragón por ejemplo como es una transnacional

nos habla de secretismo que es opaco no no se preocupe que es opaco le estoy diciendo váyase usted a la página web de la comisión europea el gobierno de españa no se entera váyase usted a la página web del ministerio de economía y competitividad es que

en la época de la información nos habla usted se van a crear tribunales

tiene usted hasta el mes de junio si le apetece y cualquier ciudadano europeo si le apetece

sobre las diferentes cuestiones que se están planteando y que se están negociando porque a día de hoy no hay ningún tratado con estados unidos de todo lo que usted ha dicho y los ciudadanos europeos a día de hoy vía página web oficial

está resultando todo este tema esa consulta pública que solo tiene usted que pinchar la página web de la comisión europea y dé su opinión me parece muy mal

tiene de plazo para participar hasta el veintiuno de junio del año dos mil catorce para mostrar su opinión la suya y la de cualquier ciudadano europeo

y si además se plantean otras cuestiones como se podrían plantear en ese hipotético acuerdo

porque igual no solo valen las competencias que tiene la unión europea para hacerlo lo que se está haciendo

más empleo intentar crear que las empresas crezcan intentar crear más puestos de trabajo a lo mejor no se llega a ningún acuerdo a lo mejor no se hace nada con lo cual usted supongo aplaudirá mucho si ese acuerdo no sale yo le diré

como país vasco ojalá se llegue un acuerdo cuanto antes que mejore los acuerdos que tenemos ahora

puedan vender más productos y en mayor cantidad en estados unidos

son que existan empresas que operan en más de un país

claro es que qué empresas vascas están exportando en estados unidos cuáles no veo a los aldeanos que bajan de la huerta

ecológicos a estados unidos es que más del diez por ciento de las exportaciones de españa a estados unidos provienen del país vasco

una gran parte de ellas son vascas a usted le parece bien o mal que vayan mejor esas empresas

o no quiere lo que ocurre es que aquí nos encontramos con el debate de siempre es decir ya sabemos que ustedes no creen en la unión europea de europa y de todo lo que se acuerden de europa

es putin y china china porque la piedra en la china y la china en la piedra y todo lo que usted quiera el juego de palabras da para muchas cosas ese es el modelo está planteando que hagamos aquí sobre todo es un modelo súper ecológico que cumple con el protocolo de kioto porque es que los chinos son los más limpios como todo el mundo sabe en materia ecológica que existe en el planeta son los que mejor lo están haciendo y nuestro modelo y lo que tenemos que copiar es eso y como se me está acabando el tiempo luego le explicaré y le diré

a ese tratado evidentemente respetando la normativa europea

y respetando los intereses europeos de los sectores económicos europeos como no podía ser de otra forma o usted se cree que las empresas europeas

pero no se crea usted que todo el resto de los europeos los alemanes los ingleses los franceses son también como nosotros

esto no es así y no es cierto que esto sea un debate de modelos usted no ha presentado ningún modelo usted no ha presentado ningún modelo usted no ha presentado ninguna a crear puestos de trabajo a mejorar las relaciones entre países usted no ha planteado nada de eso usted habla de soberanía que es lo que nos ha venido a hablar aquí

y nos pone como ejemplos además de que los tratados que tiene estados unidos son fatales para el empleo en estados unidos y de repente dentro de todo este concepto los yanquis nos iban a invadir

en uno de los tratados estos de libre comercio que tiene estados unidos se han perdido puestos de trabajo en estados unidos bueno pues mire usted no lo sé si se han perdido o si no se han perdido

que si se llega a un acuerdo en esta materia hoy en día en europa se van a crear muchos puestos de trabajo y españa en esas previsiones

de esos doscientos mil puestos de trabajo que se pueden crear españa es el cuarto país

sí gracias presidenta yo agradezco al señor matute su franqueza

ni en el día ni en por qué la comparecencia se produjo el lunes para ser concreta que para empezar a decir que el grupo socialista va a rechazar la propuesta que ha presentado bildu porque es contraria a todas las acciones que hemos llevado a cabo al menos los socialistas

trece de junio el partido socialista obrero español presentó una proposición no de ley en el congreso de los diputados

a apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre estados unidos y la unión europea ambicioso

beneficioso de ahí que no podamos apoyar sus dos primeros puntos los de su iniciativa ni el rechazo al proceso de negociación ni a los contenidos que vertebran el acuerdo entendiendo por tales los objetivos de la negociación

a los tres pilares sobre los que se intenta construir ese acuerdo el acceso a los mercados las barreras comerciales no arancelarias y las oportunidades y desafíos globales del siglo veintiuno

es el crecimiento económico y el empleo a ambos lados del atlántico a través del comercio y la inversión

estamos ante una empresa de auténtica importancia estratégica y política

económica bilateral ya es la más grande del mundo una asociación transatlántica de comercio e inversión ambiciosa y general supondría una ganancia para la unión europea de ciento diecinueve mil millónes de euros al año

una vez que se aplicase plenamente el acuerdo final podría suponer un incremento de las exportaciones de la unión europea a los estados unidos en un veintiocho por ciento ganando sus exportaciones de bienes y servicios ciento ochenta y siete mil millónes de euros adicionales

en lo que respecta a españa este acuerdo también resultaría beneficioso teniendo en cuenta que estados unidos

y su quinto proveedor mientras que estados unidos ocupa el tercer lugar en las inversiones españolas hay setecientos empresas españolas presentes en territorio norteamericano

hay cuatrocientos once empresas vascas que exportan a estados unidos sesenta y uno empresas están implantadas en estados unidos con setenta y tres implantaciones a través de filiales o delegaciones

euskadi es la segunda comunidad autónoma exportadora a estados unidos y es el tercer destino de nuestras exportaciones euskadi es la primera comunidad inversora de españa en estados unidos y es el primer destino de nuestras inversiones en el exterior por tanto la mejora del comercio entre europa y estados unidos

para las empresas vascas bildu también nos solicita a través de su iniciativa apoyar el mandato de comercio alternativo y sus exigencias

de ese mandato de comercio alternativo dice que este documento ha sido desarrollado a través de un amplio proceso de consulta con la sociedad civil de toda europa

el mandato de comercio alternativo no coinciden necesariamente con todos los puntos de este documento

sus líneas generales se considera que este es un documento en constante evolución una invitación para que otros grupos se sumen al debate sobre el futuro de la política de comercio e inversión

no nos parece ni razonable ni serio plantear o hacer el planteamiento de un apoyo a este mandato cuando es un documento que no

la concreción de sus planteamientos y además porque

lo que se plantean son alternativas al sistema comercial actualmente implantado en europa como tal sin tampoco demostrar con datos por qué ese es el sistema alternativo la unión europea es verdad que ha llegado a múltiples acuerdos

ha llegado a acuerdos con áfrica con el caribe con el pacífico con el cariforum

está en revisión también el acuerdo con el consejo de cooperación de los estados del golfo también europa ha suscrito acuerdos de carácter bilateral con otros países como corea y canada existen acuerdos de libre comercio de la unión europea con américa latina y está negociándose el tratado con mercosur con brasil uruguay y paraguay unas negociaciones que como todo tiene altibajos parece que

en curso dichas negociaciones por lo tanto múltiples acuerdos de cooperación también con méxico con chile es decir que este no es ni un acuerdo nuevo una importancia una relevancia mayor por el ámbito que ocupa y por las expectativas económicas y de empleo que plantean mi grupo es de la opinión de que un acuerdo de este tipo tiene aspectos positivos

en la comparecencia del lunes pasado porque la complejidad de dicho acuerdo hace muy difícil también dar satisfacción a todos los intereses que se puedan plantear estos acuerdos comerciales son por tanto complejos y difíciles algunos tardan mucho tiempo en levantar el vuelo y algunos ni siquiera lo consiguen

o de divergencias o de luchas de interés o de luchas de poder pero desde luego se están tratando y se tratarán en las negociaciones

no se va a dejar ninguno de lado porque pueda resultar más o menos agradable a las partes pero el acuerdo como tal no existe todavía se lo decían anteriormente

hay acuerdos en cuáles hay divergencias y de qué naturaleza son esas divergencias el parlamento europeo advirtió al ejecutivo comunitario y a los países que componen la unión europea que deberán tener en cuenta su opinión para obtener su imprescindible ratificación del acuerdo y esto no es un hecho baladí

no es importante el papel del parlamento europeo porque decide casi en último lugar ya y es decir dónde está el problema en cuándo decide el parlamento europeo o toma esa decisión de ratificar o no

o en que realmente puede de verdad adoptar la decisión sabemos que a los que están en contra del tratado no les conviene o no les gusta

europeo pero sin embargo ese veto se ha dado y ha sido una realidad como por ejemplo en el acta es decir en el

de datos bancarios con estados unidos por lo tanto hay un papel que juega europa intereses europeos intereses españoles intereses también vascos de empresas

y las negociaciones y los debates que se han realizado y que se están realizando entorno a la regulación que es otro de los temas que usted comentaba aquí se basan y se basarán en el principio fundamental de que

las protecciones que ambas partes hayan adoptado respecto de los consumidores del medioambiente de la salud o de la seguridad el objetivo en ningún caso es negociar a la baja

y no lo digo yo lo dice la propia comisión europea en esos informes y datos que está sacando en su página web

ya señala cómo las disposiciones que velan por la protección de las inversiones ha constituido una parte integral

suscritos por los estados miembros de la unión europea desde finales de la década de mil novecientos sesenta

la comisión pretende introducir mejoras en dos ámbitos aclarar y mejorar las normas sobre protección de la inversión y mejorar el funcionamiento del sistema de solución de controversias

para mejorar en aquello que no haya sido positivo para europa han sido cuatro las rondas de negociaciones que se han llevado acabo en este tema y algo que se achacaba a esas reuniones era la opacidad de las mismas aquí se ha comentado

y que la sociedad civil debe participar activamente en las mismas yo creo que eso se ha ido mejorando reunión tras reunión y en la última reunión que se celebró en marzo los negociadores confirmaron

ni una menor regulación de la protección del medioambiente ni una disminución de la seguridad para los consumidores y también se va a dotar de mayor protagonismo a la pequeña y mediana empresa y en eso sí que euskadi además está muy pero muy interesado es decir que poco a poco se va encontrando cauce

y contar con todos los puntos de vista en unas negociaciones que como decía antes son muy complicadas a pesar de la disposición de las partes nosotros no vamos a estar solo expectantes y vigilantes porque el acuerdo

en el modelo social europeo ni de su normativa pero lo que tampoco compartimos es su premisa señor matute la premisa que al menos ampara su iniciativa de que un tratado es lo peor que puede ocurrirle a europa

betikoa al final os cobijáis en la simpleza del discurso guay

las disfunciones del sistema sois vosotros y haciéndolo sin ninguna dificultad dialéctica

un par de cucharadas de intereses ocultos de las corporaciones o trasnacionales

en genérico que evidentemente existen porque hasta la fecha en la historia de la humanidad nunca se ha podido encontrar lamentablemente la vacuna contra la injusticia y listo ya está hecho el discurso

que haya entre nosotros quien considere que un pacto que nos puede colocar en el centro geográfico de un mercado que pretende neutralizar el polo económico que representa china sea intrínsecamente y por ello mismo malo solo

la campaña europea del otro modelo una campaña que colocareis con facilidad en determinados ámbitos solo con mencionar

con que digáis monsanto con que digáis fracking y con que digáis transgénico

hecho a eso se le llama populismo y no es más que la frivolización de la política o sea diría yo esta mañana se ha mencionado en algún otro debate pues un ejercicio neto

que sepamos y creo que lo dijo la consejera en su interpelación solo podemos hacer verdaderas políticas de reparto de riqueza y de justicia social si tenemos recursos y no digo si tenemos riqueza porque parece que la palabra riqueza está anatomizada en determinados ámbitos muy bien solo podemos repartir riqueza si tenemos recursos

pozos de petróleo nuestra única fuente de recursos sigue siendo

las empresas sean transnacionales sean lo que sean

esas que dan trabajo y que deben de empezar a dar más trabajo que el que dan a día de hoy

tienen que jugar en el mundo globalizado les guste o no y para eso tienen que competir porque es va de suyo y para eso sin duda tienen que vender

no es para nosotros evidentemente el modelo no lo es pero sí puede ser si se hace bien y entendemos que europa debe de tener gente capacitada para defender sus propios intereses

no es el modelo sí puede ser un instrumento seguro que tendrá sus claroscuros

positivo sin exageraciones pero positivo con lo cual

y no de las corporaciones no de las transnacionales no de los lobbies

eskerrik asko presidente andrea hay definiciones que ahorran muchas palabras y yo le agradezco sinceramente la última expresión de la vaguada del pozo de petróleo probablemente ha sido no del todo intencionada pero yo creo que ha definido claramente

para qué pensar en las renovables para qué pensar en la sostenibilidad ambiental mejor sigamos con las energías fósiles bueno déjeme déjeme terminar no se ponga nerviosa además no me molesta que diga bolivariano tampoco me molesta que me llamen demagógico ni maniqueísta

he alzado la voz para señalarles de ninguna manera a mí determinadas formas de hacer política y no solo a mí parece que cada vez más a más ciudadanos y ciudadanas nos saben muy lejos

la pomposidad parlamentaria que señala como demagógico o maniqueo cualquier planteamiento que se aleja

siempre ha habido injusticia no hay modelo perfecto no me vale porque la suficiencia en la injusticia es el sostenimiento de la misma

eso es lo que ustedes propagan es decir vamos a minorizar vamos a hacer que nuestros pobres sean un poco menos pobres que los de al lado pero siempre ha habido pobres

siempre ha habido clases esa es la lectura que nos separa y lo siento mucho que les suene a un discurso arcaico pero son sus políticas y no las nuestras las que nos están haciendo

suene tan actual en el siglo veintiuno y como usted bien señalaba tenga cada vez más gente dispuesta a comprarlo

no como la mercantilización de la vida que desde otras instancias se hacen por centrarme en las cuestiones que se han señalado yo me alegro

la vida en gipuzkoa no haya sufrido un revés terrible

sus consecuencias se noten tanto yo creo que eso también alivia toda esa carga de duda que se hace sobre las políticas de bildu estaría bien que se lo aclare al señor ortuzar también para que no siga hablando de corea o para que no siga hablando de las chapuzas de bildu porque usted que las sufre directamente como guipuzcoana ya dice que en el día a día la cosa tampoco es tan insoportable tan difícil de llevar quizás sean cositas de la campaña electoral también

matizada con respecto a la intervención de la consejera en la interpelación anterior porque es la misma secuencia que siguieron con la cumbre de la troika era maravillosa tampoco estamos muy de acuerdo

queremos dejar claro que no estamos de acuerdo con ellos hoy ustedes están haciendo lo mismo empezaron hace un mes diciéndonos que era maravilloso que no podríamos vivir sin un acuerdo como el que se necesita firmar con

y seguramente dentro de un tiempo cuando venga todo lo que tiene que venir que es la liberalización de los servicios públicos que es la entrada en la sanidad porque yo le voy a hablar de un ejemplo para que no vea que solo me voy al fracking y otras cosas a usted le parece razonable que los laboratorios farmacéuticos

una teoría esotérica pueda elevar el tiempo de vigencia de las patentes de diez a veinte años impidiendo el acceso a medicamentos en forma de genéricos a una gran parte de la población cree que eso no es empobrecer a la población pues eso se va a hacer con el acuerdo

y eso no viene en las actas que me recomendaba que leyera el señor damborenea porque las doscientos reuniones mantenidas con las trasnacionales no vienen en las actas para mi desgracia y no sé si para la suya que vive más tranquilo se hablaba de la propuesta y del modelo y

hace cuatro días hemos presentado ciento cincuenta medidas concretas para

el señor egibar muchas veces nos dice dónde está nuestro programa ahora están ahí las ciento cincuenta medidas las tienes son fáciles de leer hablan de la economía local del desarrollo endógeno hablan de los circuitos cortos de la producción a través de la economía social y cooperativa ahí yo creo que hay un modelo diferente a este modelo de trasnacionales que no las menciono como si fuera la bicha si no fueran realmente la bicha además no soy yo el que pierde el tiempo o sus energías

es que un montón de asociaciones algunas muy respetables incluso para ustedes les acaban de interponer una denuncia por vulneración sistemática de los derechos humanos a las trasnacionales a monsanto y a todas esas que usted me ha mencionado pero como le decía el verdadero debate es la privatización de la sanidad porque estados unidos necesita una veta de negocio y porque en europa la sanidad era un servicio público

de las patentes y los medicamentos genéricos al que se le va a abrir la veta para que las empresas

en qué beneficia a las empresas vascas que están operando en estados unidos con las leyes que haya en estados unidos que en europa suframos las leyes que hay en estados unidos en qué les beneficia en teoría no tendría que beneficiarles en nada y únicamente una cuestión

que dice desconocer una gran parte de lo que pueda resultar finalmente es decir usted me dice que el documento

y le recuerdo esto es algo muy recurrente en la izquierda los proyectos permanentemente inacabados pero ese argumento usted no lo utiliza para de alguna manera atacar al acuerdo trasatlántico

ya que y no podía ser de otra manera el señor damborenea ha mencionado a putin a china y a otras cuestiones creo que yo he hecho una crítica a china que usted aquí no ha hecho probablemente porque

usted qué defensa más potente he hecho yo de china que son ustedes los que les salvan

pero sí ha mencionado a putin yo no estoy para nada de acuerdo con putin y creo que en eh bildu será fácil coincidir en que no estamos para nada de acuerdo de putin pero una opinión personal sí se lo voy a decir

que la que está manteniendo su gobierno y la unión europea defendiendo una auténtica persecución contra antifascistas eskerrik asko

no cabe esperar otra frase como con la que ha terminado su intervención ahí le dejo y me vuelvo a centrar al tema que usted nos había traído si no le importa mire usted el acuerdo si es que se llega a hacer algún día

es una recomendación de los técnicos y si se llega puede crear empleo en europa y en estados unidos no sé por qué usted se niega o por qué su grupo se niega a que se estudie la posibilidad de llegar a un acuerdo porque eso es lo que está usted hoy planteando aquí cuando usted habla de lobbies

a la hora de ir a adoptar alguna medida no se reúne con los sectores afectados

ustedes toman decisiones sin reunirse con la gente afectada lo lógico

cuando va a llegar a un acuerdo de un tratado se reúna

con todos llámeles usted lobbies llámele usted como le de la gana como usted quiera se tendrán que reunir con el sector farmacéutico sí y con el agrícola

para ver las cosas que se acuerden si les afectan bien mal o regular

en fin ya le he dicho antes que todo el mundo no es tan tonto como usted se piensa y los alemanes menos es decir pues bueno como los alemanes no son tan tontos y los ingleses tampoco y los franceses tampoco nosotros sí somos todos tontos para usted

en fin a que sus empresas salgan perjudicadas en beneficio de las americanas déles un margen de confianza a esos que usted algunas veces pone como ejemplo mire usted uno de esos lobbies es el agrícola

yo le voy a decir lo que dicen hablando de campaña electoral pues el manifiesto que ha sacado la copa cogeca que es uno de los mayores sindicatos agrarios europeos

lo que dicen de esto le voy a decir lo que dicen las exportaciones europeas de productos agrícolas representan un valor anual

de euros tres barra cuatro partes a estados unidos

que los estados unidos son el principal mercado de los productos agrícola de calidad

y que evidentemente les interesa que se amplíe y se llegue a ese acuerdo evidentemente también con unas condiciones por ejemplo

a los agricultores europeos les preocupa por ejemplo que en estados unidos no se reconocen hoy las denominaciones de origen y eso hace perder valor a los vinos europeos pues una de las cosas que pretenden y quieren que se incluya a usted igual le parece mal pero en fin supongo que a los viticultores alaveses les parecerá fantástico de los nervios y no se tiene usted que ir a no sé qué sitio del mundo mundial nos quedamos aquí en euskadi en casa con la gente a la que les afectan estas cosas y lo que plantean estas cosas

lo que plantean es que deben cumplirse las normas de producción europeas y exigírseles también a los productos americanos pues claro como no puede ser de otra forma lo que es absurdo es que venga usted aquí como dice que es campaña electoral a hacer demagogia me importa un comino

busco la excusa del posible tratado de libre comercio pero lo que usted no me ha dicho es que si tenemos que cerrar o no el grupo mondragón o sí tenemos que dejar de comprar a la transnacional

tenemos que dejar de comprar productos de ese lobby transnacional que es el grupo mondragón

tenemos que cerrar esas empresas transnacionales que se dedican a explotar a los trabajadores americanos en estados unidos

no me ha contestado antes contesteme alguna vez en su momento a su portavoz también se lo pregunté

nunca la contestan causalmente en gipuzkoa hay bastante transnacionales de estas que ustedes se quejan tanto que dan bastantes empleos en gipuzkoa

porque usted lo que se opone es que haya un tratado con estados unidos le da igual lo que diga porque ha día de hoy no existe nada

no nos da igual nosotros sí estamos porque hay más empleo sí estamos porque se produzca más empleo no solo aquí sino también en estados unidos nos parece fantástico pero especialmente nos parece fantástico que se pueda producir más empleo en el país vasco y por eso nos parecerá fenomenal

se puede llegar a esa firma de ese tratado porque las condiciones que han puesto o hemos puesto los europeos son las necesarias y las convenientes yo entiendo

pero en fin otros que pertenecemos al grupo mayoritario en europa y que sí sabemos qué intereses defendemos

si gracias presidenta el comercio exterior no suele ser un tema que destaque en los programas electorales pero

en centrar buena parte de esa campaña en las negociaciones entre estados unidos y europa

mire los socialistas vascos somos conscientes de que la envergadura de esta empresa de este asunto es un rasgo especifico del tratado y que es normal que tenga que existir preocupación es absolutamente normal

ninguna cuestión especial yo lo que no comparto es

la estrategia de la gran alarma social

un tratado cómo finaliza un acuerdo este acuerdo es verdad es diferente a cualquier otro acuerdo

que se haya llevado a cabo en europa pero por su envergadura por lo que contiene

para el crecimiento económico y el empleo y desde luego europa y estados unidos jamás han negociado o han llegado a este nivel de interrelación y de intercambio en las negociaciones

en acuerdos comerciales y yo dejo la referencia de ese informe de septiembre del año dos mil trece porque en un tono coloquial y demagógico usted hablaba de la opacidad y de que no se conocen informes y que a veces incluso en la interpelación

difícil comprensión y yo sí me gustaría

porque como decía en un tono pedagógico desentraña el posible acuerdo las bases de ese acuerdo

normativo para contestar las dudas que se van generando se expone el por qué y el cómo de ese acuerdo se rebaten las inquietudes sobre los niveles de seguridad de sanidad de protección

los intereses de las empresas se dice si se elimina o no la normativa en qué aspectos en qué fases se habla también de los cambios técnicos de su relación con la protección normativa

y también a las pequeñas y me parece que es un documento a tener en cuenta cuando se dice que en fin que poco se conoce es muy difícil de conocer este tratado y esto está en internet

los socialistas creemos que una asociación de comercio e inversión trasatlántica debe incluir

para poder impulsar intereses mutuos sin comprometer estándares europeos

en ese juego estamos los socialistas y el parlamento europeo es la institución elegida por la ciudadanía que tiene que ratificar ese acuerdo de lograrse el mismo

asuntos relacionados con el comercio exterior de la unión europea lo hizo con acta lo hizo también cuando suspendió el intercambio de datos bancarios con estados unidos y

la opinión del parlamento para obtener su imprescindible ratificación del acuerdo y este acuerdo deberá respetar el modelo social europeo es lo que recordó el presidente de la eurocamara martin schulz para que no se convierta en un dumping social por tanto demos tiempo al tiempo

y si culminan será entonces cuando los socialistas al menos los socialistas españoles exijamos a nuestro grupo parlamentario en europa la vigilancia precisa y la adopción de aquellas decisiones

el equilibrio entre el crecimiento económico de europa y el modelo social europeo y no vamos a apoyar el documento del mercado alternativo de comercio decía usted usted habla de que está inacabado y sin embargo

sí lo apoya nosotros apoyamos que se iniciaran las negociaciones esa fue la proposición no de ley en el congreso de los diputados que se apoyaran las negociaciones

no podamos apoyar el mandato de comercio alternativo y esperemos

a la hora de pronunciar palabras pues utiliza con cierto grado de frivolidad ese tipo de acusaciones que no hay quien las aguante ni siquiera el señor matute porque el modelo del partido nacionalista vasco es el de crear una sociedad

hacer que nuestros pobres sean un poquito menos pobres que los pobres de al lado no señor no señor euskadi ha conseguido en los últimos años no solo de mano o con el trabajo del partido nacionalista vasco pero en gran medida sí

y unos ratios de cohesión social

muchísimos de los países del mundo yo lo que no ha contestado el señor matute es cuál su modelo y yo realmente tengo

pues estaba trayendo la imagen del modelo bolivariano

ustedes sabrán y tienen todo el derecho del mundo a elegir cuál es su modelo

desarrollo endógeno endógeno que se origina o nace en el interior como las células que se forman dentro de otra eso dice la rae de endógeno

es cierto supongo que su modelo es endógeno aunque por cierto a raíz de esos ciento cincuenta medidas que han presentado me hizo gracia en alguna red social leer un comentario que decía jo cuántas ideas donde no gobiernan y que pocas donde sí gobiernan porque es verdad que gipuzkoa no es tan insoportable yo vivo en gipuzkoa y me encanta y no es tan insoportable es un poco sin fundamento o

básicamente que a raíz

se ha vuelto como leit motiv de los guipuzcoanos yo creo que está empezando a conformar parte de nuestro propio adn

curioso y si no ha sido eso ha sido pues el ir suprimiendo o aminorando las partidas para la promoción económica que tenía consignadas la diputación

creo que se ha adjudicado las obras del segundo tramo de la variante de antzuola cuando voy para allí que soy concejal paracaidista

pero bueno allí parece que bildu no es tan sensible

de macroestructuras que se están produciendo allí y bueno aparte de eso pues poco más del modelo guipuzcoano

la mención que ha hecho de la supresión de justicia universal a cuenta de la presión china

porque es un buen ejemplo de que no es necesario firmar acuerdos mercantiles para que se produzcan situaciones en las que determinados estados sientan su poderío transnacional

a tener que tomar medidas que van

pues porque se han erigido en primeras potencias mundiales más allá de

y lo que hacen es ejercer ese poder de facto y

para centrar la campaña electoral han encontrado un tema que les parece fácil y atractivo y dialécticamente

y lo van a utilizar yo creo que de una manera un tanto apocalíptica y a mí eso me parece frívolo como lo he dicho en la primera intervención

hay una cosa que me gustó de la comparecencia de los profesores de la upv del otro día y es la mención que hicieron al principio de la simetría y en eso estoy de acuerdo

evidente entre los convenios que dan cobertura

a nivel mundial que son en sí mismo muy poco coercitivos y sí muy declarativos y los pactos de mercado

que son automáticamente aplicables con carácter legal y con valor coercitivo y en eso sí estoy de acuerdo totalmente de acuerdo es una reflexión muy interesante

presidenta buenas tardes señorías hoy hablamos de pensiones hablamos de la remisión y la revalorización de las pensiones

oportuno y en un lugar adecuado momento oportuno porque estamos en un momento en

la propaganda del gobierno la publicidad del gobierno de españa

habla de la recuperación y esta es una cámara que cuando se habla de la recuperación tiene que acudir rápidamente a ver qué parte de esa recuperación beneficia a la sociedad que representa y como esta cámara también representa a los pensionistas y jubilados del país vasco obviamente en solidaridad con ellos y en solidaridad con el conjunto de los pensionistas del país parece razonable que queramos hacer un posicionamiento político de esta cámara para acudir

queremos hacerlo en primer lugar porque en estos momentos se puede decir que los pensionistas junto con los desempleados son las personas más desprotegidas más desfavorecidas por la situación económica que venimos arrastrando desde hace

en segundo lugar lo queremos hacer porque como he iniciado si hay recuperación esta se tiene que notar y se tiene que traducir en políticas activas para aquellas personas que están en peor situación y en tercer lugar queremos tratar este asunto porque

el procedimiento y el contenido que se ha usado es

altamente peligroso altamente perjudicial y que por lo tanto merece también una reflexión de nuevo para seguir insistiendo en una idea o en una perspectiva política

que entiendo que debiéramos en esta cámara la inmensa mayoría asumirla y es que

bajo una fórmula unilateral del gobierno de españa en ausencia del diálogo y el consenso que se debe producir en el pacto de toledo

de todas las fuerzas políticas económicas y sociales para resolver todo lo concerniente al sistema público de la seguridad social y por lo tanto que esta cámara apele o reivindique

que en realidad es el papel del diálogo y el consenso me parece que es absolutamente oportuno según el programa de estabilidad

para el tiempo dos mil trece dos mil diecisiete ese programa de estabilidad habla de cómo va a seguir reduciendo el déficit público en españa y sitúa fundamentalmente a los pensionistas y a los parados considera que la creación de empleo que se pueda producir va a generar menos gasto en asistencia a los parados

en el gasto público y también considera que las pensiones por el sistema de revalorización que se ha planteado en estos momentos unilateralmente también va a significar un menor gasto por parte de los recursos públicos en realidad

aunque luego a la hora de expresarlo aquí lo dice de otra forma lo que le ha remitido a bruselas en ese programa de estabilidad es que los pensionistas de aquí al dos mil diecisiete perderán aproximadamente

de su poder adquisitivo el señor montoro que todo el mundo sabemos que es una persona muy ingeniosa cuando construye frases la verdad es que es un mirlo blanco señora garrido usted me lo confirma con su movimiento de cabeza hace unos meses

aquellas pensiones o mejor dicho cuando la inflación no supera el uno por ciento ni las pensiones ni ningún salario

este ingenio y esta facilidad para crear frases importantes por parte del señor montoro se desmonta fácilmente

se explica que lo que consumen fundamentalmente los pensionistas y jubilados teniendo en cuenta la cuantía de sus pensiones pues es el consumo

el agua la calefacción el transporte público los medicamentos

ese conjunto de bienes y servicios ese conjunto de consumo ha crecido aproximadamente en los últimos tiempos entre un diez y pico un once por ciento

si efectivamente todos los bienes y servicios y todo el consumo que tuvieron los pensionistas estuvieran en una inflación todos ellos

quizás esa frase lapidaria del señor montoro se podría acercar a la realidad

la verdad es que aquellas cosas que más consumen por necesidad vital

tienen unos costes y unas subidas una inflación demasiado exagerada para la capacidad adquisitiva por lo tanto es bastante razonable que si los pensionistas van a perder tres puntos de aquí al año dos mil diecisiete si además en su cesta de compra los productos que caben has subido muy por encima de lo que se espera

como anuncia el gobierno a bombo y platillo todos los días hay una recuperación

en este país qué menos por solidaridad en este país qué menos por justicia social en este país que esa recuperación llevarla a los pensionistas y jubilados llevarla a las personas que más lo necesitan decía también el señor montoro también en otra ingeniosa frase porque la verdad que es un hombre con unas virtudes extraordinarias haciendo frases

también que la recuperación entra o se reconoce cuando entra en casa cuando entra a casa de cada uno bueno hagámosle caso al señor montoro aquí lo que estamos planteando es que

entre en las casas de los pensionistas y jubilados que son varios millónes de ciudadanos en este país y que por lo tanto si hay una recuperación tienen todo el derecho a beneficiarse de esa recuperación bien este es un poco el planteamiento de esta

realmente sencillo y bastante razonable para los tiempos que corren hay recuperación

que más necesitan de esa recuperación y por otro lado reconstruyamos ese tiempo y ese lugar de diálogo de entendimiento de encuentro como es el pacto de toledo para abordar algo tan importante

para el bienestar de esta sociedad y algo tan fundamental para la calidad de vida

que es lo que en su tiempo se dio en el pacto de toledo y que en estos momentos se está pretendiendo hacer saltar por los aires por eso hemos presentado esta

no queremos que el debate sobre la recuperación en este país sea un debate artificial sea un debate solamente de propaganda y publicidad que si hay recuperación se hagan actos concretos que demuestren esa recuperación

en su responsabilidad yo quiero escuchar aquí después

confirmar que efectivamente existe esa recuperación y que por lo tanto están en disposición de atender esas necesidades sociales tan acuciantes como son las de los pensionistas

yo creo que es importante que esta cámara se posicione en contra de este ajuste sobre el déficit que está haciendo en estos momentos el gobierno de españa y la mayoría conservadora de la unión europea

para seguir apretando al gasto público en españa y para hacerlo además en este tipo de políticas sociales

de denunciar esa situación y de decir que no es ese el camino de la política europea del futuro de la política

hay que hacer a partir del próximo período y que en cierto modo empezaremos a construir desde hoy que se inicia la campaña electoral

absolutamente injusto y una profunda barbaridad una profunda insolidaridad que el ajuste del déficit público se quiera hacer a costa de parados y pensionistas por eso presentamos

ha tenido la posición cercana favorable también del partido nacionalista vasco con una leve modificación que la hemos presentado en esa enmienda transaccional creo que en esta cámara hay una mayoría que rechaza

una amplia mayoría que rechaza esta forma de

que rechaza también el que se sustituya el encuentro el diálogo y el acuerdo por la imposición

por eso yo espero que esta enmienda que ha sido suscrita en principio por los dos grupos más allá de que luego hay otros planteamientos políticos colaterales que aparecen

con todos los demás con independencia de que luego hay matices o detalles que no están necesariamente relacionados con lo que le estamos planteando sobre la revisión de las pensiones o sobre el sistema el procedimiento

con otras cuestiones más de política de autogobierno o más de crear políticas sociales alternativas o compensatorias etcétera estos son planteamientos que aparecen en las enmiendas de otros grupos

no le tiene por qué afectar porque en eso coincidimos con el conjunto de los grupos

esta propuesta que la que se limita al partido nacionalista vasco y al partido socialista de euskadi muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

en el dos mil once se congelaron las pensiones sin embargo el ipc subió el dos coma cuatro por ciento en el dos mil doce el ipc subió dos coma nueve por ciento pero las pensiones no subieron en la misma proporción y en el dos mil trece

por lo tanto durante años durante estos años los pensionistas han perdido poder adquisitivo de forma considerable y según esta ley lo seguirán perdiendo

de las pensionistas las más afectadas son las mujeres

y mujeres es abismal es decir las mujeres cobran de media

y esto es consecuencia una vez más de las múltiples diferencias que hay en el mercado laboral en particular y en el reparto del trabajo en general la diferencia salarial entre hombres y mujeres

todas estas y muchas más son la causa de que también las mujeres sean las más desfavorecidas dentro del segmento de las personas pensionistas

y beneficia a una minoría elitista no han concluido aún parece que no va a terminar

retraso de la edad de jubilación modificaciones en el cálculo de la pensión aumentando la exigencia de los años cotizados y aumentando los años de referencia para calcular la prestación

con todo esto todavía no les parece suficiente ahora bajo la excusa del impulso al empleo han publicado el decreto ley tres barra dos mil catorce

sí muchas gracias presidenta buenas tardes a todas y a todos voy a intentar ser breve conciso concreto

por qué votaríamos a favor de los tres primeros puntos de la transaccional que han firmado el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos quiero decir en primer lugar que estoy en fin totalmente de acuerdo con el discurso planteado por el señor más teniendo en cuenta que el señor prieto no ha hecho referencia al punto cuatro

no compartimos como después explicaré estamos de acuerdo con rechazar esta reforma por ser una reforma injusta por ser una reforma

tal como escucho desde aquí porque desde aquí se escucha todo que efectivamente es muy censurable la forma unilateral el gobierno de españa para llevar acabo esta cuestión una cosa es que se tenga mayoría absoluta para aprobar determinadas leyes más allá de que siempre es necesario el acuerdo el consenso y el diálogo con el resto de partidos políticos pero una cosa en todo caso es tener mayoría absoluta determinadas leyes pero otra cosa es tratar de aplicar esa mayoría absoluta para un tema tan sensible como del que estamos hablando hoy que es el sistema público

evidentemente compartimos no solamente el rechazo a la reforma por lo injusta que es sino también y quizás especialmente la forma de hacer de este gobierno en relación a esta cuestión y por lo tanto también la llamada compartida

al pacto de toledo como forma apropiada para buscar el máximo consenso y el máximo acuerdo por lo tanto rechazo a la reforma por injusta y por la forma

al acuerdo lo cierto es que el factor de sostenibilidad tal y como queda planteado en la ley supone confrontarlo con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y lo hace de tal manera que en esa confrontación pierda siempre el mantenimiento adquisitivo por otro lado la normativa del factor de sostenibilidad pretende actuar exclusivamente sobre el gasto recortando las prestaciones

los cuales como se está demostrando quedan a la decisión del gobierno por ejemplo la reciente medida de la llamada tarifa plana de cien euros de cotización

esta reforma supondrá una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y hay que dejar claro que es la fórmula que el gobierno de españa libremente ha elegido para reducir el déficit público podía haber utilizado otro tipo de medidas pero ha utilizado precisamente esta fórmula y ha decidido utilizar

quienes evidentemente salgan perjudicados para lograr ese déficit o esa reducción del déficit público una fórmula por lo tanto injusta que empobrece a una parte importante de la sociedad por lo tanto y en lo fundamental y hasta aquí de acuerdo con los tres primeros puntos de la transaccional que ustedes han firmado y a partir de aquí

que parece que el partido socialista se olvida de que el primero que actuó unilateralmente sobre la revalorización de las pensiones

que fue por cierto el mismo que introdujo la necesidad de introducir de sostenibilidad y por otro lado en lo que se refiere al punto cuatro cabe hacer algún comentario lo cierto es que el señor prieto no ha dicho nada sobre la cuestión yo quiero hacer algún comentario una cosa es que el estatuto de gernika recoja

de que euskadi asuma la gestión y estamos hablando de la gestión del régimen económico de la seguridad social cierto pero otra cosa es que

al resto de grupos o a otros grupos para pedir al gobierno de españa que realice esa transferencia es distinto una cosa es que esté recogido en el estatuto y otra cosa es que nosotros vayamos a pedir al gobierno de españa

automáticas y exigen el acuerdo el diálogo entre ambos gobiernos y porque además en nuestra opinión esta transferencia

no aportaría nada a euskadi y por otro lado esta exigencia legítima en todo caso y perfectamente respetable que ustedes hacen no tiene

con el razonable y justo deseo de mantener para nuestros pensionistas y jubilados unas pensiones justas no tiene absolutamente nada que ver nosotros no vamos a apoyarla por esto último que he dicho y por lo anterior porque no queremos pedir al gobierno de españa que realice esa transferencia no nos parece

añadirían a cualquier tipo de propuesta en relación a esta cuestión aunque ya digo que nada tenga que ver con el factor de sostenibilidad ni con el mantenimiento de las pensiones por lo tanto esta cuestión no tiene nada que ver con el mantenimiento o con la mejora del sistema

lo tuviera que no la tiene en buena lógica y en coherencia con los otros puntos recogidos debería ser tenida en cuenta y valorada en el pacto de toledo pero ya digo que no la tiene en absoluto en conclusión y para terminar estaríamos dispuestos a votar a favor de los tres primeros puestos puntos de la transaccional
en defensa de los pensionistas y de los jubilados vascos y de los restantes pensionistas y jubilados españoles nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

eusko abertzaleak taldearen jarrera jakitea gaur eztabaidatzen gauden ekimenaren inguruan nos han sorprendido fundamentalmente de la propuesta inicial del partido socialista por un lado que se presente ante el parlamento vasco cuando en todos los casos

haciendo referencia al gobierno de españa a hacer diferentes cosas que no se haya presentado últimamente una iniciativa en el mismo sentido en el congreso de los diputados órgano competente al respecto cuando además como ya le han dicho también los representantes de otros grupos

y respecto a la petición expresa realizada al parlamento vasco es reiterativa puesto que esta cámara como ya se ha dicho también ya se ha pronunciado contra la ley veintitrés barra dos mil trece reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social impuesta al margen del pacto de toledo

y rechazaremos la reforma introducida en la ley veintitrés barra dos mil trece reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social

creemos que la modificación del sistema de pensiones debiera haberse realizado en la comisión del pacto de toledo entre los agentes sociales y partidos políticos buscando apoyos para la reforma planteada como se ha hecho en otras ocasiones en este sentido

como siempre se había hecho antes el máximo consenso social y político esta modificación rompe la estructura del modelo vigente hasta la fecha del sistema público de pensiones

los recortes a través de los dos factores de sostenibilidad están siendo dramáticos para los pensionistas y también lo serán a futuro por ello el punto dos de la transaccional al gobierno del estado a que vuelva al pacto de toledo y en dicho marco ponga las medidas necesarias para que los y las pensionistas y jubilados y jubiladas recuperen una fórmula que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas

que por justicia les corresponde pusimos de manifiesto y hoy reiteramos que la anunciada subida de un cero coma veinticinco por ciento en las pensiones

la bajada del poder adquisitivo de los y las pensionistas

como bien saben el ipc sube muy por encima de dicha cantidad por lo tanto nos parece cuando menos

vulnerable como el de los pensionistas es un auténtico disparate

el rechazo a la ley veintitrés barra dos mil trece como ha quedado claro a lo largo de nuestra intervención

desde que tuvimos conocimiento de la modificación puesta en marcha por el gobierno de rajoy hemos sido críticos muy críticos con dicha modificación por injusta y porque afecta

directas de comunicación con las asociaciones y grupos de personas mayores y pensionistas

aquellas medidas que afectan a las políticas de protección social de hecho el departamento de empleo y acción social mantiene un diálogo permanente con las mismas aquí en euskadi y ha conseguido siempre dentro de la legalidad y sus competencias mejorar las pensiones del colectivo de viudas por ejemplo que gozan de una mayor y mejor protección en euskadi que en el estado

respecto a la petición de creación de un fondo presupuestario para llevar a cabo el pago de la paga compensatoria reiteramos que no es posible a día de hoy le voy a repetir las preguntas que le hice en su momento a la señora arrondo y hoy se las repito a usted señora cuál es la valoración económica de dicho fondo presupuestario de cuánto dinero hablamos de dónde creen ustedes que debiera quitarse para crear dicho fondo

sin base real es más un deseo casi me atrevería a decir una utopía pero sin base económica alguna nos parece una falta de responsabilidad total esta actitud como ya se lo hemos dicho en infinidad de ocasiones

solicitan que el gobierno asuma la gestión total de las pensiones asumiendo para ello las competencias y medios que sean necesarios nos gustaría

se refieren concretamente con lo de asumir las transferencias cuál es el procedimiento para ello dónde

se refieren a una asunción unilateral de competencias sinceramente señora zulaika estaría encantada de ver sus explicaciones y encaje jurídico a estas cuestiones tan concretas que le hemos preguntado

hemen zaudeten sailburuok otra vez hablamos de pensiones pero en realidad señor prieto no hemos hablado de pensiones porque ustedes han hecho una referencia

reforma incluida la últimas de las reformas incluidas en materia de pensiones por el partido popular y también llama la atención que el partido

en el que se está empezando la recuperación económica y no presentara estas iniciativas más lejos

fue el que congeló por primera vez las pensiones en la historia de este país y la verdad es que sí le citaré a zapatero pero si también prefieren les puedo citar a rubalcaba

que se tomaron en ese momento decisiones equivocadas y que sin duda han llevado

el gobierno del partido popular se encontrara la situación que se encontró una herencia absolutamente desastrosa y que tuviera que tomar medidas

medidas estructurales y emprender reformas estructurales para salir de la situación tan delicada

y otras tantas cuestiones por lo tanto ustedes plantean una iniciativa para rechazar la reforma realizada precisamente para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de las pensiones una reforma que además mira al futuro que intenta garantizar el equilibrio económico financiero y

que arrastra el sistema esas disfunciones que ustedes fueron incapaces de subsanar

porque si algo pretende esta nueva reforma igual que las anteriores es garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y que el sistema sea

decisiones decisiones que si se hubieran tomado en su momento no estaríamos hoy como estamos

como estamos porque ahora estamos un poquito mejor de como estábamos en el año dos mil once cuando ustedes perdieron en gobierno en definitiva decisiones que mantienen y que velan por mantener los principios esenciales de la seguridad social un modelo público de prestación definida contributivo y de solidaridad intergeneracional

en las últimas décadas ha llegado hasta el diecisiete por ciento y en el año dos mil cincuenta y dos será del treinta y siete por ciento

el número de pensionistas es actualmente de nueve millónes y pasará a ser de quince millónes en el año dos mil cincuenta y dos

el sistema de la seguridad social dedica hoy más recursos que nunca al pago de las pensiones y prestaciones de la seguridad social y ha crecido

desde el año dos mil desde el año dos mil ocho el sistema ha perdido tres millónes de cotizantes por la crisis y al mismo tiempo

el ochenta por ciento se perdieron en los gobiernos del partido socialista por cierto y también desde dos mil ocho se han incorporado

los datos que he expuesto y que conoce este gobierno y que debía haber conocido el partido socialista estaban provocando un insostenible desequilibrio en las cuentas de la seguridad social ante el que sin duda no se podía permanecer impasibles las situaciones exigía tomar decisiones

sobre diagnósticos certeros decisiones sin dilación que ha tomado y sigue tomando el gobierno del partido popular

que se ha encontrado como la desastrosa herencia recibida o todas las cuestiones derivadas por las cosas que no hicieron en su momento

de las pensiones partían de un diagnóstico poco realista

y cuando estaba haciéndose ese anuncio ya se estaba latente el déficit de dos mil diez entonces también ustedes decían por eso hacía referencia al tema de los diagnósticos certeros y que es una cuestión importante

alcanzaría el recurso al fondo de reserva hasta el año dos mil veinte y esta previsión ocurrió porque hubo que acudir al fondo de reserva en el año dos mil doce

como siempre con rotundidad sin que algunos se enteraran o no se quisieran enterar y fallaran de lleno en sus previsiones y decisiones sobre este tema

con décadas señorías si los gobiernos anteriores los gobiernos socialistas hubieran anticipado una reforma de calado

seguramente no estaríamos como estamos porque está claro que hay que estar preparados para enfrentar los retos y desafíos del futuro

es necesario incorporar medidas adicionales a las previstas en las leyes en vigor

como es el caso de factor de sostenibilidad por lo tanto nada de que no se haya respetado el pacto de toledo se han seguido sus recomendaciones

han ido en la línea de la implantación de un factor de sostenibilidad

la normativa aprobada reguladora del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social de la que usted hoy no ha hablado nada de nada

ha habido diálogo de acuerdo a las recomendaciones del pacto de toledo el gobierno ya pidió a un grupo de expertos independientes una propuesta concreta sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones ha habido diálogo con los agentes sociales

durante la tramitación del proyecto de ley otra cosa es que hayan existido actitudes de bloqueo

últimamente ustedes saben mucho ya ustedes hablaban en la ley de dos mil once

por lo tanto esta era una previsión que ustedes mismos recogieron en la ley que aprobaron como le decía la propia recomendación segunda contenida en el informe de evaluación y reforma en el pacto de toledo

otros índices de revalorización esta regulación que se ha efectuado en esta ley ajusta la pensión inicial de jubilación de manera que el importe total que perciba a lo largo de su vida un pensionista

número de años y que previsiblemente tendrá mayor esperanza de vida sea equivalente a la que recibe el que se jubile en un momento anterior

estimada en ambos momentos por lo tanto el factor asegura el riesgo asociado al incremento de la longevidad

del sistema son ustedes señores del partido socialista los que tienen el triste récord de haber sido los únicos

las pensiones en la historia de nuestro país con esa congelación los pensionistas sí que perdieron poder adquisitivo perdieron tres puntos de poder adquisitivo señor prieto tienen el triste récord también señores socialistas de haber dejado el sistema de la seguridad social en déficit en dos ocasiones en el año mil novecientos noventa y seis

con esa herencia tan desastrosas pero es que le digo más

hubo que pedir un prestamos para atajar las pensiones

cada vez que gobiernan ustedes señores socialistas dejan la caja como la dejan y luego tiene que venir el partido popular a arreglar las cosas por si les parece también poco

y no separaron como tenían que haberlo hecho las fuentes de financiación de la seguridad social por tanto si alguien ha incumplido el pacto de toledo han sido ustedes señores socialistas el partido popular

sin dicho fondo de reserva hoy tendríamos que estar pidiendo un prestamo para pagar puntualmente las pensiones ha separado las fuentes de financiación y en el año dos mil doce

la democracia las pensiones en ningún caso se han congelado han subido con los gobiernos del partido popular la equidad

que se piden a una generación de cotizantes pueda ser correspondidos cuando estos lleguen a ser pensionistas el factor de sostenibilidad que se aplicará a las pensiones de jubilación a partir del año del dos mil diecinueve garantizará que generaciones diferentes

de toda su vida todo esto lo estableció como le decía la recomendación segunda del pacto de toledo aprobado en el congreso de los diputados

sobre el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización es la clara respuesta a los retos que nos plantea

no es suficiente con pagar las pensiones hoy sino hay que garantizar cómo pagarlas mañana y pasado mañana

el futuro nos preocupa y por eso se adoptan medidas para que los jóvenes de ahora que son los que soportan el sistema con sus contribuciones y su trabajo tengan la seguridad por justicia y por equidad como decía de que el día de mañana se les cubrirá también con el sistema y podrán cobrar sus pensiones

las pensiones no se van a congelar nunca más como sucedió con el partido socialista subirán como decía se han blindado de congelaciones posibles y el sistema gana en sostenibilidad y la situación económica que como ustedes saben está mejorando parece que los únicos que no lo ven es el partido socialista lo reconocen todos los organismos

a alguna voz más autorizada por lo tanto se están tomando y acabo señora presidenta medidas reformas de carácter estructural eficaces y realistas para poder mirar el futuro para ganar en credibilidad y confianza que es lo que estamos haciendo y desde luego lo que no hicieron ustedes señores socialistas cuando

señora presidenta quiero en primer lugar hacer una réplica conjunta a todos los grupos que han hecho

a la señora garrido para ver si entiende algo de lo que estamos planteando en este punto de debate

la señora arregi que nosotros en el año dos mil once congelamos las pensiones y efectivamente

en el año dos mil once congeló las pensiones medias altas no congeló las bajas las bajas

y le puedo asegurar que si alguien está profundamente arrepentido de que aquello sucediera así somos la inmensa mayoría de los socialistas lo hemos pagado muy caro

y ahora si quieren hablamos de la actualidad o si quieren también nos volvemos al pasado nos metemos en el túnel del tiempo y nos disfrazamos todos de la edad media entonces hablemos de lo que traemos hoy aquí hablemos del momento actual de la recuperación económica

y de cómo esa recuperación económica se traslada a la ciudadanía porque ustedes no pueden hablar de recuperación económica y decir que hay que seguir congelando porque ustedes también congelan pensiones no pueden seguir planteando una congelación de pensiones

cuando ustedes en el programa que han presentado sobre la estabilidad económica a la unión europea han planteado que de aquí al dos mil diecisiete los pensionistas van a perder como menos tres puntos

que los pensionistas no solamente pierden el diferencial entre su revalorización y la inflación

su pensión a consumir y a gastar en bienes y en servicios que algunos de ellos han subido entre el diez y el veintiuno por ciento y ahí está

los medicamentos etcétera como consecuencia de las políticas de su gobierno oiga llevan ustedes dos años y medio gobernando

solo a estudiar la historia y a fastidiar a la ciudadanía solamente a estudiar lo que hizo los gobiernos socialistas y a fastidiar

a su responsabilidad que aquí hemos venido a plantear dos cosas por un lado que queremos recuperar el diálogo el encuentro el consenso

que se lo piden todos los partidos que se lo pide la inmensa mayoría de la ciudadanía

es que queremos que si hay una recuperación entre en las casas de las personas que más necesitan esa recuperación porque esa recuperación es fundamentalmente publicidad

pero cuando van a bruselas y cuando plantean el programa de estabilidad

van orgullosos en ese entendimiento con los conservadores europeos diciendo que se va a reducir el gasto público como consecuencia de que se va a destinar menos dinero para los desempleados y menos dinero para los pensionistas

yo entiendo que usted venga aquí y dedique diez minutos a hablar del señor zapatero y del histórico del partido socialista

usted puede hacer lo que le de la gana ahora la mejor demostración de que emplear diez minutos en hablar de lo que no se trae a cuestión aquí es simplemente una fuga

es eso usted tendrá que hablar de su responsabilidad ustedes gobiernan españa sí o no

sí o no ustedes en estos momentos están en el entendimiento en el diálogo en el pacto de toledo sí o no

esto es lo que se trae a esta cámara un posicionamiento sobre eso porque nos parece una infamia nos parece absurdo nos parece una injusticia profunda que

en todos los medios de comunicación de hablar de la recuperación que esa recuperación

con cifras en qué consiste la recuperación explíquenos para que

para que sepamos exactamente qué es lo que quieren explicar explíquenos para qué esa recuperación para quién es esa recuperación

y no haya dinero para los pensionistas y no haya dinero para los desempleados

este es el problema este es el dilema y esta es su responsabilidad lo que pasa que no se

un error del año dos mil once usted tendría que reconocer aquí innumerables errores empezando por las mentiras de su programa empezando por las contradicciones

yo no le quiero recordar cuantos millónes de puestos de trabajo iban a crear y díganselo al señor pons que él es el que se acordará de la cifra

y sin embargo cuántos parados han creado y así sucesivamente todas las variables

social pero en fin no es de eso de lo que estamos hablando estamos hablando de la revalorización de pensiones y de que el sistema público de pensiones nos compete nos afecta

y por eso queremos participar en el pacto de toledo todos los ciudadanos a través de sus representaciones en cómo tienen que ser las pensiones del presente y las pensiones del futuro conteste a eso conteste si está dispuesta a seguir manteniendo esta reducción de pensiones a los pensionistas con este sistema del cero coma veinticinco por ciento con el que ustedes aquí dicen una cosa

y todo el mundo sabe que van a perder como mínimo tres puntos de poder adquisitivo en este periodo enfréntese a eso

y nosotros con él de lo que hizo en el dos mil once ahora usted enfréntese a su responsabilidad a lo que hace a lo que hace mal
a lo que es antisocial a lo que es contrario al interés de los ciudadanos eskerrik asko prieto jauna y ciudadanas

begiratzen en cuanto a la enmienda transaccionada entre el

en el primer punto rechazan la ley veintitrés barra dos mil trece y nosotros también lo hacemos pero además rechazamos el resto de

se seguirán llevando acabo y que sobre todo están afectando

más desfavorecidos como son en este caso las personas pensionistas respecto al segundo punto nosotros no nos quedamos únicamente en la retórica vacía o en referencias o en peticiones

al pacto de toledo que

sino que hacemos propuesta no les ha parecido tan concreta como pensábamos

una propuesta al gobierno vasco para que se cree un fondo presupuestario así lo hicimos como ha dicho la señora arregui para que se cree un fondo presupuestario con el que poder compensar el poder adquisitivo de las personas pensionistas durante estos últimos años así como la paga complementaria y esto

dinero hay el problema es cómo se reparte ese dinero a dónde va ese dinero y esa es la cuestión y esa es la respuesta

bai eskerrik asko berriz ere legebiltzarburu andrea se nota que hoy empieza la campaña para las europeas

partidos estatales tanto el partido popular como el partido socialista

a los pensionistas ahora los dos

supongo que buscando el voto y este debate casi solo

viene a corroborar lo que decía en mi primera intervención que nos sorprendía que se hubiera presentado este debate en el parlamento vasco y en este momento para hablar

de montoro y de compañía creemos que este debate se tenía que haber tratado en el congreso de los diputados aunque no tenemos ningún problema en debatir y en

respecto al tema de asumir la gestión total de las pensiones galdera batzuk egin dizkizut ea zelan egiten den hori eta ez didazu erantzun ezta cuál es el procedimiento si están hablando de una asunción unilateral

hay que hacerle un pase foral a la legislación existente galdera erantzun gabe berriz ere gauzak bota baina inolako zehaztasun gabe eta

eta upyd taldeari a nosotros nos parece muy importante el punto cuatro de la

y dice que no tiene mucho que ver con el tema de las pensiones tiene que ver tanto como que estaba en la iniciativa original transaccional acordada el día tres de octubre a nosotros y siempre lo hemos venido además así

viniendo y solicitando que esta transferencia que está recogida en el estatuto de

sea de una vez ya transferida la gestión de la seguridad social que sea transferida a euskadi primero porque es de justicia porque es una ley orgánica aprobada en el congreso y porque además es evidente y ha quedado demostrado por activa y por pasiva que cuando las instituciones vascas

las transferencias se hace con una eficacia y una eficiencia mucho mayor por lo tanto seguiremos solicitando la transferencia cuantas veces sea necesario hasta que

gracias señora presidenta lo que sí me queda una cosa clara es que si

puesto la mitad del ímpetu que usted ha tenido hoy en esta tribuna señor zapatero no nos hubiéramos encontrado la situación que se encontró el gobierno

se nota que algunos no solo hoy empieza la campaña sino que están muy nerviosos

de la recuperación económica al partido socialista le molesta y le irrita de forma clara

y dejaron la herencia que dejaron seguramente porque con dos tardes no tuvieron suficiente

de pagar las pensiones de garantizar el sistema de la seguridad social de gastar de garantizar el estado

ese empleo que subió ese desempleo o los empleos que se perdieron con ustedes del ocho por ciento en el año dos mil siete al dos mil once con el veintitrés por ciento

esos tres millónes de cotizantes que se perdieron pero de los que se perdieron el ochenta por ciento cuando ustedes gobernaban

congelaron las pensiones en la historia de este país y precisamente con esta reforma lo que se va a conseguir es que ya nunca más el gobierno que sea el gobierno de turno que sea sea el del partido popular

no tenga la tentación de congelar las pensiones qué nos hablan del pacto de toledo cuando dejaron el déficit en dos ocasiones en déficit de la seguridad social

pedir un crédito para pagar las pensiones del mes siguiente es que ahora

y pasado mañana pero qué nos hablan ustedes de déficit cuando nos dejaron un déficit que aquí también engañaron a la ciudadanía porque una cosa es engañar al gobierno de turno pero engañaron a los ciudadanos cuando el déficit era tres puntos mayor que el que nos dijeron y alcanzó la cifra de noventa mil millónes de euros claro también hay que decir

las tomaron con la complicidad absoluta del partido nacionalista vasco que no solo aprobó los presupuestos del señor zapatero

como son la de las congelaciones de las pensiones o por ejemplo también la de rebajar el sueldo a los funcionarios mire las reformas

están trayendo sus frutos y resultados y están siendo reconocidas por expertos

y personas que están al frente de organismos importantes que no sé la credibilidad

que les merece a ustedes pero desde luego sí al partido popular el último por cierto

candidato socialista a la presidencia de la comisión europea que ha felicitado al candidato claro no creo que pueda felicitarle por muchas cosas a la señora valenciano por concluir las reformas que tenía que hacer este gobierno para

y anima a seguir con las reformas anima a seguir con las reformas que no sé si son precisamente

al respecto y mire precisamente gracias a esas reformas y a esas medidas

el desempleo aumentando el empleo no tanto en la comunidad autónoma del país vasco y eso señor lehendakari sería objeto de una reflexión y objeto

gracias a todo eso ha sido posible que en el último año las pensiones de nuestros pensionistas hayan subido más que el ipc y que se hayan recuperado

ese valor adquisitivo de tres puntos que se perdió con la congelación por primera vez en la historia esa congelación que hizo el partido socialista y señor prieto la verdad es que hago una previsión no me gusta jugar a

pero me imagino que en el próximo periodo de sesiones nos presentará la misma iniciativa pero creo que usted va a estar más nervioso y su ímpetu va a ser mayor porque la recuperación económica será mayor habrá más empleo y habrá más cotizantes a la seguridad social y por lo tanto estará más garantizado el sistema público de pensiones que es por lo que apuesta el partido popular
el estado del bienestar nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea

buenas tardes señorías desde que se inició la crisis ya vamos para la segunda legislatura

han comparecido en bastantes ocasiones colectivos de trabajadores representantes sindicales comités de empresa en razón de situaciones empresariales de cierre de despidos colectivos y han venido siempre buscando amparo buscando

ustedes saben que el parlamento poco puede hacer en esas circunstancias más allá de prestar justamente su apoyo testimonial y prestar su solidaridad o su apoyo

con carácter general luego la verdad es que los resultados de las gestiones que puedan surgir de las negociaciones pueden ser bien desiguales

como laminaciones arregui una empresa emblemática del territorio alavés

en conflictos con amenaza de cierre con despidos con la judicialización

judicialización que además se ha resuelto favorablemente a los trabajadores en los casos en los que se han planteado y que desde luego a la luz de los datos que conocemos pues arrojan desde luego una situación por la cual la empresa seguramente se encontrará en situación de dificultades eso nadie lo puede

pero ciertamente en estas situaciones límite es cuando más se necesita precisamente el consenso el acuerdo la cercanía la información

las primeras víctimas los primeros damnificados de las medidas que se tomen situación empresarial de este tipo se plantea por eso ellos concurrieron en esta cámara comparecieron en comisión y pidieron en su momento

una declaración o pidieron un pronunciamiento unánime a poder ser de esta cámara que le diera mayor fuerza mayor empuje a la misma el texto

que se presenta hoy consecuencia además de una transacción con el partido nacionalista

exactamente el texto original que el comité de empresa nos facilitó pero precisamente por las dificultades que tiene articular acuerdos y consensos ha habido que

tratando de ser en lo posible lo más fieles a la misma para buscar precisamente ese consenso lo que viene a decir esta proposición no de ley es en primer lugar cómo no que este parlamento expresa su solidaridad con los trabajadores afectados por estos cierres además trabajadores que después de dos años

que desayunaban hoy con la noticia de que nuevo la empresa les comunica un despido colectivo

de las plantas de urbina y vitoria lo cual es desde luego una pésima

en segundo lugar el parlamento le insta al gobierno a la dirección de trabajo a que ejerza sus mejores oficios para intermediar con la dirección de la empresa en orden a buscar las soluciones

el parlamento también valora positivamente la trayectoria y la ejecutoria del comité de empresa que en todo momento se ha mostrado en disposición de buscar acuerdos ha tenido sensibilidad suficiente para entender cualquier posible arreglo

por la parte económica o propietaria de la empresa en otro orden de cosas también se plantea y esto vale para este caso y para otros semejantes

de la legislación aplicable no se hagan ejercicios antisociales y abusivos del derecho

y por último se dice también que el acuerdo que aquí se tome se envíe a las partes concernidas al gobierno a la dirección de la empresa a los trabajadores y demás

esperamos que esta proposición no de ley que ahora se debate va a tener entiendo el respaldo de toda la cámara y por lo tanto

más cuestiones sin embargo recordar en este caso que los titulares de esta mañana traían al mismo tiempo la noticia del despido colectivo para los trabajadores de laminaciones arregui y junto a él aparecía la noticia de que

se plantea una situación parecida pero con acuerdo de las partes esto demuestra que efectivamente hay modos y maneras bien distintos de articular estas situaciones en el mundo empresarial

y sea capaz de entender que no se pueden resolver los problemas de las empresas despachando y quitándose de por medio

que ya se ha visto en anteriores litigios que no estaban debidamente planteadas aquí hay una serie de datos

teniendo beneficios aumentando sus ventas con unos gastos sociales realmente bajísimos porque los datos que dan a mí me parece que en una unidad de explotación gastos de

eso como dice una de las sentencias no constituye por sí mismo una medida que vaya a garantizar la viabilidad porque son porcentajes de gasto en la cuenta de explotación bien pequeños por todo eso celebramos

y de lucha en defensa de sus puestos de trabajo y del mantenimiento de la empresa

es un día con un significado importante significado importante para los trabajadores y trabajadoras de laminaciones y también para una buena parte de la sociedad de araba que ha apoyado y apoya las justas reivindicaciones de estos trabajadores y trabajadoras

lo digo por dos cuestiones la primera ya la he mencionado hoy hace dos años que dichos trabajadores y trabajadoras

celsa atlantic aunque más conocida por laminaciones arregui se vieron abocados y abocadas a realizar el primer día de huelga en defensa de sus derechos la segunda cuestión también se mencionado desde esta tribuna ayer mismo recibieron

que va a iniciar un nuevo procedimiento de despido colectivo para la totalidad de sus empresas otra vuelta de tuerca más que la empresa

va a realizar esta vuelta de tuerca exige más que nunca hoy el compromiso de todos y de todas también de este parlamento también

a las intenciones de esta empresa dejar en la calle a los trabajadores y a las trabajadoras desmantelando las empresas que tiene en álava bi mila hamabiko apirilean enpresak

en la empresa abriendo un duro camino judicial aún sin finalizar hace unas semanas el tribunal supremo resolvió

anulando la sentencia que consideraba procedentes noventa y uno despidos quedando nuevamente a la espera de una nueva sentencia

de vulneración de la legalidad dicha sentencia legalidad que a día de hoy

defenestrar la negociación colectiva dejando a una parte en absoluta condición de debilidad pero no es suficiente para esa patronal insaciable y por eso incluso se saltan esa legalidad como es el caso

mientras tanto muchos trabajadores y trabajadoras han sido despedidas en dicha empresa

la situación de celsa atlantic es de total abandono hoy con la última comunicación por parte de la empresa se da un paso más en esta dirección en un intento claro de desmantelamiento y de acabar con los puestos de trabajo todo esto como se ha dicho también anteriormente y mucho más nos contaron los representantes de dichos trabajadores y trabajadoras miembros del comité de empresa en la comisión de empleo y políticas sociales

pudimos conocer preguntar compartir y valorar la situación todos mostramos nuestra preocupación por la situación que estaban viviendo y les mostramos nuestro apoyo en dicha comisión también nos hicieron unas peticiones entre otras cuestiones que este parlamento les diese su apoyo y trabajase para resolver el conflicto la proposición no de ley que presentamos conjuntamente eh bildu y el partido socialista es consecuencia del compromiso que adquirimos no es una propuesta nuestra es una propuesta de los trabajadores y trabajadoras

que hicimos nuestra que hemos hecho nuestra y la presentamos legebiltzar honek ezin du beste alde batera begiratu eta bere eskuhartzea beharrezkoa da

pues el parlamento muestra su solidaridad con los trabajadores

en esta proposición no de ley su apoyo en la defensa que están realizando de sus puestos de trabajo y de la continuidad de la empresa en araba el parlamento

todos los medios a su alcance y refuerce su labor de intermediación

que no es un medio únicamente que hay muchos y que tendremos oportunidad de poder hablar de ello valoramos positivamente este parlamento valora positivamente la actitud una y otra vez manifestada por el comité de empresa y los trabajadores y trabajadoras de celsa

y por ello insta a la dirección a tomar a responder a esa actitud positiva de forma proactiva y a iniciar las negociaciones para llegar a un buen fin a una situación acordada muestra su rechazo a cualquier ejercicio antisocial y entendemos y abusivo que se pueda hacer incluso de la legalidad

esta empresa la está llevando y las sentencias lo corroboran una y otra vez

haciendo realizando un seguimiento de las negociaciones en esta empresa y con el objetivo de que lleguen a buen puerto dichas negociaciones la situación mejore y la empresa retire incluso la ultima propuesta que se ha realizado es por lo que eh bildu ha firmado

esta transaccional nos comprometemos a seguir trabajando y peleando a vuestro lado junto a los trabajadores y trabajadoras de laminaciones para frenar

que pretende la empresa celsa atlantic sabemos badakigu gaur

sailburua legebiltzarkideok arratsalde on denoi bueno ya se nos ha leído en dos ocasiones

tres reflexiones fundamentalmente en relación a ello en primer lugar

con sus familias como se ha dicho aquí este está siendo un proceso muy largo

nos ha recordado el señor itxaso les hemos tenido en este parlamento en una comparecencia el veinticinco de junio del dos mil doce de la pasada legislatura en la comisión de desarrollo económico pudimos estar con ellos también comparecencia del pasado catorce de marzo en la comisión de empleo y políticas sociales y vivienda y hoy estamos con ellos en este pleno

solidarizarnos sin duda con ellos como hemos hecho en estos casos

y durante todo este proceso para nuestra sociedad hoy el empleo es la prioridad

la prioridad de este gobierno es y seguirá siendo

en el debate de investidura el lehendakari estableció como prioridad del gobierno la creación de las condiciones y los estímulos precisos para la generación de empleo con especial incidencia en ese momento también y en relación directa con este caso en la defensa del empleo existente una

en un programa marco por el empleo y la reactivación económica con una estrategia por el empleo una estrategia a corto plazo con seis áreas setenta y nueve medidas concretas además de un planteamiento a medio largo plazo con una estrategia por la reactivación

concretas todo ello todo en un programa marco con concretas asignaciones presupuestarias se nos decía hoy que hay situaciones limites nos decía el señor itxaso efectivamente esta es una situación límite es un

y en relación al segundo párrafo una herramienta una herramienta que es la herramienta de la intermediación

consejero aburto desde el inicio de la presente legislatura la prioridad de este consejero ha sido y está siendo potenciar y posibilitar el diálogo entre las partes

y qué es lo que puede hacer el gobierno en estos casos qué herramienta puede utilizar puede realizar una labor de intermediación

me gustaría detenerme en esta función de intermediación hemos desarrollado el texto transado y me gustaría pararme un poco en este segundo párrafo inicialmente

respeto a la autonomía de las partes para pactar lo que mejor resulte a sus intereses quiénes son esas partes quiénes son esas partes legitimadas sin duda la dirección de la empresa

hay una total imposibilidad de suplantar a esas partes entonces cuál es la función del gobierno en qué se materializa la función del departamento la función de la dirección del trabajo se materializa en posibilitar el acercamiento entre las posturas de las partes

el departamento se encuentra con un escenario como es este caso de relaciones laborales muy deterioradas con una profunda desconfianza entre las partes

nos encontramos con una profunda reforma de la legislación que ha significado un recrudecimiento de la conflictividad no voy a entrar

de esta técnica de intermediación intervención siempre a petición de parte puesta en contacto con la otra parte equipo intermediador etcétera

me gustaría concretar que esta herramienta que puede parecer muy teórica no no lo es

es real me gustaría recordar aquí ejemplos de utilización de esta herramienta hoy también nos ha puesto algún otro ejemplo el señor itxaso ejemplos reales que han afectado a personas concretas a trabajadoras y a trabajadores de esta sociedad estoy hablando de la utilización desde la dirección de trabajo de la intermediación en la solución de los conflictos de gasolineras de bizkaia de cementos lemoa de nanuk ejemplos estos

en los que la dirección de trabajo ha liderado esa intermediación pero también ha utilizado esta misma herramienta desde la cooperación como en los casos

y en breve referencia a las concretas actuaciones en el caso de

me gustaría destacar la auténtica implicación de la dirección de trabajo en dos detalles en la rápida reacción en el tiempo y en los recursos utilizados

un sindicato propone al departamento que actúe como mediador

hay una reunión de cinco sindicatos con el director de trabajo el delegado de trabajo de araba y el responsable de relaciones laborales reacción

y en recursos la empresa

de una plantilla ajustada y flexible el departamento intentó profundizar en la intermediación pero se encontró con una posición de falta de voluntariedad argumentando la empresa el hecho de estar pendiendo de resoluciones judiciales cuestión que también se ha recordado hoy

en marcha en noviembre de dos mil trece con la misma respuesta negativa esto no es una mera

se ha hecho y como décimos y quiero subrayarlo como se dice en el párrafo segundo

que continúe en ese empeño sin duda continuará en ese empeño una tercera reflexión es el acuerdo no voy a incidir más

desarrollado anteriormente hoy lo que sí quiero plantear

que también ha desarrollado el señor itxaso asistimos a acuerdo entre partidos entorno a este texto sin duda cualquier acuerdo entre partidos

es un acuerdo positivo es una cuestión positiva aun siendo positiva no es una cuestión a celebrar y no es una cuestión a celebrar por la cuestión

por las personas a las que hoy nos referimos un deseo para finalizar que este texto acordado sea germen del futuro acuerdo

se ha alcanzado nosotros también lógicamente manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras

también lo hacemos con las dificultades que la empresa haya podido pasar pero en cualquier caso aquí está el texto hemos seguido con preocupación esta situación

saludamos el acuerdo entre los proponentes el enmendante y sobre la propuesta que

trabajadores ya se ha hecho referencia a los puntos de la enmienda de transacción nosotros en este momento nos queda apostar por un diálogo constructivo y realista
que haga que las negociaciones lleguen a un buen fin para todos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzunen txandara pasatuz

lau cuatro solicita la puesta inmediata en libertad de todas las personas detenidas o condenadas por mantener relaciones sexuales consentidas con personas del mismo sexo reales o sospechadas cinco

y de otra índole para prohibir y eliminar el trato discriminatorio basado en la orientación sexual o la identidad de género en cualquier nivel de la administración de justicia

por las autoridades competentes con prontitud e imparcialidad y que se obligue a sus autores a rendir cuentas y a comparecer ante un tribunal en este sentido

quiere hacer especial hincapié en los casos mencionados en el punto uno de la presente declaración

algo que las mujeres y niñas de todo el mundo deben poder hacer sin miedo a la violencia las escuelas son y deben ser lugares seguros donde las niñas y los niños puedan aprender y crecer en paz con independencia de su género lengua nacionalidad o religión sin olvidar ni querer obviar que la violencia contra las mujeres es una realidad en todo el mundo queremos resaltar este hecho por su especial gravedad es un ataque brutal e inaceptable que exige una respuesta contundente e inmediata

gabe askatzeko insta al gobierno nigeriano a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para proceder a la liberación de las jóvenes a adoptar con urgencia medidas para asegurarse la liberación de las jóvenes y garantizar que puedan continuar su educación en un ambiente seguro